por la que miles de personas fueron desalojadas de sus casas durante los últimos años no son compatibles con la directiva europea de protección de los consumidores que se aprobó en el año mil novecientos noventa y tres a partir de esa sentencia los jueces que están examinando si ha habido cláusulas abusivas en los contratos hipotecarios

el proceso de ejecución e impedir un desalojo asimismo el tribunal fija una serie de principios sobre cómo deben interpretar los jueces que una cláusula

el tribunal superior de justicia en junio de este año también dictó sentencia ejemplar creando jurisprudencia dice el supremo que las cláusulas suelo solo serán válidas cuando se cumplan los requisitos de especial transparencia

y añade que las personas consumidoras deben ser informadas de forma clara y destacada además prohíbe a las entidades bancarias afectadas que vuelvan a utilizar

las cláusulas suelo en los mismos términos kontsumobide sancionó en el año dos mil doce a una caja por usar una cláusula suelo techo abusiva esa entidad impugnó vía recurso la sanción pero la sentencia

dio la razón a kontsumobide y confirmó la sanción porque consideró abusiva la cláusula suelo lo cierto es que de alguna manera

hay una coincidencia de los distintos tribunales de las sentencias dictadas entiendo que también entre los grupos políticos que cohabitamos en esta cámara y también de la sociedad de que ha habido y sigue habiendo cláusulas claramente abusivas en la concesión de créditos de hipotecas y otra serie de productos bancarios

la proposición no de ley que presentamos los socialistas en la que instamos al gobierno vasco a que elabore y ejecute

autónoma para detectar y sancionar el uso de esas cláusulas abusivas así como remitir a esta cámara en un plazo de tres meses las enmiendas presentadas por eh bildu son de adicción y así las hemos considerado incorporándolas ambos puntos en la enmienda de transacción agradecemos por tanto sus aportaciones

enmienda a la totalidad presentada por el grupo nacionalistas vascos

de kontsumobide para informar a los consumidores sobre cómo detectar

la vigilancia así como la información asesoramiento etcétera

entendemos que tampoco tiene mucho sentido en la respuesta que dio el departamento de salud y consumo el día doce de septiembre relativa a esta cuestión ya indicaba que kontsumobide atiende las consultas relativas a las cláusulas suelo y que sigue el procedimiento habitual en el ámbito de las reclamaciones

estudio de una posible existencia de infracción y sanción también en el ámbito de la información con la publicación en la página web de las sentencias y noticias de interés hoy mismo me ha llegado un correo electrónico anunciándome que kontsumobide publicaba en su página

en cuanto al segundo punto que presenta el grupo nacionalistas en el que el parlamento vasco insta al colegio notarial del país vasco a advertir expresamente a los consumidores

de las posibles cláusulas abusivas contenidas en los contratos hipotecarios

tampoco cobra mucho sentido no obstante quiero apuntar una cuestión y es que la sentencia del tribunal supremo antes referida alude a la falta de transparencia que afecta a muchas personas

sin saber que contenían cláusulas suelo a pesar de que se les haya explicado ante notario dice la sentencia porque el tribunal supremo dice que eso no es suficiente

es así el tercer punto de su enmienda sí tiene mucho sentido y por lo tanto lo hemos incorporado en la enmienda de transacción y en definitiva quiero agradecer a ambos grupos la colaboración creo que hemos llegado a un buen acuerdo transaccional

la aprobación del resto de grupos a la propuesta por mi parte nada más y muchas gracias eskerrik asko sarasua andrea

para empezar parezco un poco renacentista porque a la mañana hablo de paisaje y a la tarde de cláusulas abusivas y no sé

hace solo cinco años en españa y en menor medida en euskadi la compraventa de vivienda no era algo extraordinario se había convertido casi en una rutina

todos tenían dinero parecía que todos eran ricos cuando realmente lo que todos teníamos eran deudas todos debíamos bancos empresas ciudadanos y administración aquel sueño de riqueza colectiva de repente se quebró aunque zapatero negara aquella crisis a partir de ahí llegaron los cuatro jinetes del apocalipsis a un tiempo las deudas se convirtieron en más deudas

deklaratu ziren llegaron los desahucios las tragedias y el rescate supermillónario de los bancos

una ruina sobre los ya arruinados hoy nos encontramos con miles de pisos vacíos en manos de bancos miles de familias desahuciadas y otras tantas

cuántas personas compraban pisos sobre plano para revenderlos en un mes y obtener pingües beneficios y tantas cosas que ocurrieron

quedando gran cantidad de los conflictos como cenizas de aquel gran momento fogoso de riqueza generalizada en manos de los jueces de esta judicialización

en sentidos variados pero en términos generales tendentes a velar por el consumidor me quedaría con dos relevantes

un futuro más transparente para todos y no las voy a comentar porque ya han sido citadas y comentadas por la señora sarasua estas dos sentencias junto con decenas de menor rango han modificado sustancialmente la situación de los consumidores

en euskadi como ya he dicho al principio la situación no ha sido tan grave lo que no quita que las diferentes administraciones

atendiendo todas y cada una de las reclamaciones que les llegan incluso con el objeto de prestar más y mejor servicio este mismo martes no hoy este mismo martes antes de saber el acuerdo al que íbamos a llegar hoy

de una manera sencilla los fundamentales aspectos de la citada sentencia del supremo y ofrecen sus servicios de intermediación explicando el modo de actuar del ciudadano y desglosando las capacidades administrativas del organismo que básicamente consisten en la posibilidad de mediar y en su caso

todo ello por cierto con un esfuerzo en ofrecer un lenguaje inteligible y divulgativo lo cual

y haciéndome olvidar que al leer las sentencias leí

qué significa ahora ha llegado el momento de restañar heridas lo aprobado hoy

aunque entiendo se requiere de una explicación con objeto de no defraudarnos resulta menester explicar que la capacidad de inspección del gobierno vasco es limitada

parece más correcto incentivar la denuncia del consumidor a través de kontsumobide para recibir toda la ayuda administrativa y jurídica que se requiera

sí permiten una inspección detallada de cada uno más aún cuando tras las sentencias ya comentadas han ido desapareciendo las cláusulas suelo no creo que lo más alentador sea malgastar energías cuando hay modos más sencillos de abordar los conflictos

como fedatarios públicos sobre ellos debería caer la carga de la prueba definitiva sobre si se informó bien o no al consumidor de las cláusulas que se dispone a contratar y firmar

que el aspecto de haber sido informado resulta clave en todas las sentencias no ha sido posible el partido socialista no lo ha querido cuando nuestra intención no era

era solo recordar una misión independientemente de lo que pueda decir la sentencia del supremo pero hemos puesto por delante la voluntad de acuerdo la búsqueda de la unanimidad que hemos entendido en temas de esta sensibilidad la sociedad nos demanda

por eso hemos firmado este acuerdo al tiempo de animar permanentemente al gobierno que apoyamos a que impulse su trabajo de vigía y mediador

porque se trata de corregir un desvarío general que arrincona a los desprotegidos

al sentenciar aquello de que la desvalorización del mundo humano crece en razón directa a la valorización del mundo de las cosas

además apelamos a la necesaria labor por parte de todos incluido este parlamento en transmitir la responsabilidad que todas las personas tenemos en lo relativo a nuestro papel como consumidores para lo que se deben regular esfuerzos en formación

el acuerdo de todos en temas de esta índole resulta didáctico en tanto muestra la voluntad de la soberanía por ayudar a quien esté en posición de desventaja sin ninguna necesidad de reprochar nada en definitiva una especie de ambición colectiva

unos más ansiosos con más interés y más poder que otros pero la colectividad

hoy toca reconstruirnos y sobre todo a los que más debilitados han salido de aquella crisis el grupo nacionalistas vascos ha estado y estará con los consumidores que no hayan sido informados convenientemente con los que hayan sido engañados y con todos aquellos que sufren para poder continuar con dignidad su recorrido vital pero no olvidemos que todo esto es consecuencia de la humana ambición que como dijo oscar wilde es el último refugio del fracaso

creo que podemos empezar recordando las cláusulas abusivas más frecuentes en los contratos hipotecarios

y miles de ciudadanos los intereses de demora aquellos intereses en los que se incurre cuando existen retrasos en el pago de las cuotas hipotecarias y que suponen en ocasiones la asfixia económica del deudor la cláusula suelo techo esta cláusula

se beneficiasen de las fuertes bajadas experimentadas por el euribor en los últimos años facua estimaba hace unos meses que nueve de cada diez hipotecados

de que su crédito contaba con una cláusula de este tipo vencimiento anticipado del prestamo se han dado casos en los que con el impago de una sola cuota la entidad ha activado esta cláusula algo que debería corregirse en la línea de otros países de nuestro entorno la finalidad del prestamo muchos prestamos hipotecarios prohíben al consumidor desarrollar actividad profesional en la vivienda o alquilarla lo que ha perjudicado también

especialmente en un momento de crisis como el actual lo que ha constituido un atentado al derecho al desarrollo económico y en ocasiones a la propia supervivencia del deudor o la cláusula fuero en algunos contratos hipotecarios la entidad impone el sometimiento a un determinado fuero

al cliente en caso de litigio a acudir a los tribunales que correspondan al lugar que conviene a la entidad financiera en definitiva son muchas las cláusulas abusivas que han perjudicado a miles y a miles de ciudadanos

alguna de ellas cláusulas abusivas que lesionan los intereses de los consumidores

la sentencia del tribunal de justicia de la unión europea que viene a decir que la ley hipotecaria española no se ajusta al derecho europeo y no lo hace principalmente porque

indefensión ante las cláusulas abusivas se trata de qué hacer para acabar con todas las cláusulas abusivas de las hipotecas y de los contratos de crédito al consumo

e ir suprimiéndolas se trata de saber si todos estamos de acuerdo en suprimirlas y dar los pasos necesarios para lograrlo en españa existen

upyd ha pedido en varias ocasiones que se regulen por ley los intereses de demora y que no puedan iniciarse procedimientos de ejecución por el impago de una sola cuota la última vez logramos el apoyo de todos los grupos parlamentarios

el partido popular y el congreso instó a regular dichos intereses pero es que upyd curiosamente ya había sacado adelante también por unanimidad

en la anterior legislatura y lo cierto es que nada se hizo por eso a veces tenemos la sensación de que quizás sea el gobierno de españa la cláusula más abusiva que sufrimos creo que el objetivo por lo tanto debería ser

identificando las cláusulas abusivas eliminando y por supuesto dar la mayor información posible al conjunto de los consumidores se trata de que el gobierno de españa impida estos comportamientos con inspecciones sanciones y una legislación más dura así como poner en marcha medidas para garantizar la protección los derechos de los usuarios no hemos presentado

pero creo que el banco de españa debería ser quien identificara todas las cláusulas abusivas para que se puedan ir eliminando lo cierto es que tanto

en la iniciativa original como lo que han planteado el resto de grupos creo sinceramente que son propuestas que son todas ellas interesantes y

enmienda de transacción que nosotros vamos a apoyar

la iniciativa original que este parlamento pudiera instar al gobierno vasco a elaborar urgentemente y ejecutar un plan integral de inspección a las entidades de crédito que operan en euskadi para poder detectar y sancionar el uso de cláusulas abusivas creo que también el resto de enmiendas las dos enmiendas presentadas planteaban

perfectamente razonables incluidas algunas de las iniciativas algunos de los planteamientos realizados por el grupo nacionalistas vascos que finalmente no se han incluido en esa transaccional obviamente estamos de acuerdo con rechazar toda práctica económica y financiera abusiva e instar al gobierno vasco a que dé los pasos necesarios para que desaparezcan inmediatamente tal como presentaba y proponía eh bildu e instar al gobierno vasco a que ponga a disposición

de los bancos todos los recursos y protección legal eficaz de que dispone kontsumobide y ya digo que también algunos de los planteamientos planteados por el grupo nacionalistas vascos nos parecían ciertamente interesantes

instáramos al colegio notarial del país vasco a advertir expresamente a los consumidores en aplicación de la legislación vigente de las posibles cláusulas abusivas contenidas

al fin y al cabo no podemos olvidar que una hipoteca es constituida como escritura pública ante un notario

para garantizar la legalidad de los contratos que se le presentan si el notario detecta la presencia de cláusulas abusivas debería rechazar el documento

que muchas veces son cuantiosas la hipoteca requiere además de la participación de un segundo alto funcionario que también percibe tasas

este califica e inscribe el documento en el registro de la propiedad sin embargo hay cláusulas abusivas que sobreviven al control de notarios

sucede porque las cláusulas abusivas para ser tales deben estar inscritas en el registro de condiciones generales de la contratación

en el registro el notario o el registrador no pueden considerarla abusiva motu propio el registro lo llevan los registradores de la propiedad

no se ha incluido finalmente en la transaccional una transaccional que nosotros compartimos y que señala

en euskadi obviamente es de sentido común que este parlamento rechace toda práctica económica y financiera abusiva y que inste a las entidades financieras

las cláusulas abusivas todas ellas aunque aquí se diga que especialmente las denominadas cláusulas suelo y abstenerse de utilizarlas en lo sucesivo en sus contratos de prestamo hipotecario con consumidores y usuarios también es de sentido común que se inste al gobierno vasco

de las entidades todos los medios y la protección legal de la que dispone

dos puntos por lo tanto de sentido común y respecto

nos parece también interesante y veremos qué va a hacer en los próximos meses el gobierno nosotros en todo caso esperamos que el gobierno elabore y ejecute el plan

cuanto antes antes de tres meses tal y como se señala la transaccional en fin una vez más volvemos a decir que esperamos que esta transaccional que me parece interesante y que saldrá

a ello nada más y gracias eskerrik asko maneiro jauna

sí gracias señora presidenta y buenas tardes a todos de nuevo debatimos en este momento una cuestión que nos preocupa a todas las instituciones y que tiene atrapados y cautivos

ni evidentemente va a ser la última de hecho la semana que viene tendremos ocasión de volver a debatir a propósito de otra iniciativa con relación

normativa europea pero creemos que en este punto es importante centrar el debate y realizar un análisis riguroso para clarificar algunos supuestos porque no es lo mismo cláusula suelo

para que la cláusula suelo tenga un carácter abusivo tiene que reunir una serie de características y lo décimos porque se ha instalado una especie de ceremonia de la confusión

de que todas las cláusulas suelo son abusiva y que por tanto todas ellas debieran de ser anuladas

nada mejor que remitirnos a la doctrina del tribunal supremo que en su sentencia de mayo del presente

aclarada en un auto en junio lo que viene es a recoger las fundamentaciones jurídicas

por el tribunal europeo de justicia y lo que viene a decir como decía es

para que una cláusula suelo debe ser anulada por considerarse abusiva y a modo de resumen porque creo que todos aquí lo conocemos para que

no haber sido negocio individualmente que la actuación del profesional sea contraria a la buena fe que exista falta de información y transparencia

además el alto tribunal declara que no es preciso que concurran de forma simultanea todas las circunstancias anteriores

incidencia la ejecución del contrato con el fin de que el consumidor pueda adoptar

no puede sustituirse esto como decía por el cumplimiento de meros formalismos carentes de eficiencia en tal sentido incluso el tribunal supremo indica que las cláusulas suelo pueden ser consideradas nulas si concurren las circunstancias citadas

de las bajadas del índice de referencia por tanto creo que todos debemos saber y conocer en el marco en el que estamos jugando para realizar un diagnóstico serio

pero a nuestro juicio es más que evidente que la situación que atraviesan millónes de personas que se encuentran atrapadas con las cláusulas suelo que yo creo que todos aquí tenemos la voluntad de que a partir de ahora

sin embargo sí que debemos decir que esta situación era a todas luces evitable si se hubiese aplicado la legislación tanto a nivel nacional como a nivel autonómico que teníamos

y daba instrumentos para haber actuado antes y por hacer

de tipo legislativo podríamos citar la ley

que ya en su artículo diez establecía que las cláusulas deben cumplir con una serie de requisitos como son la concreción

y que deben basarse en la buena fe y el justo equilibrio y que se deben excluir las cláusulas abusivas definiendo estas

en los que lo ha dictaminado el tribunal supremo y por tanto que no voy a reiterar

ocho declaraba como derechos básicos la protección de los legítimos intereses económicos y sociales en particular

de cláusulas abusivas en los contratos y a nivel autonómico también teníamos fórmulas el estatuto de personas consumidoras y usuarias establece que se debe garantizar en las condiciones generales de contratación de las cláusulas abusivas contra la buena fe y el justo equilibrio de las contraprestaciones por tanto

que nuestro marco jurídico nos proporciona y nos ha proporcionado en el pasado las herramientas necesarias para que no se hubiera producido este abuso masivo y colectivo en que han sido objeto miles de personas y por ello

qué es lo que ha fallado y a nuestro juicio lo que ha fallado han sido los mecanismos de control y en esos mecanismos de control hay que incluir tanto al banco de españa

no les voy a aburrir y no les voy a decir las frases que decía el gobernador

nombrado por primera vez en la historia de forma unilateral por el partido socialista a favor

y solo les voy a decir una cosa son un factor que favorece la estabilidad financiera

público y que la supresión de los suelos tendría efectos catastróficos

de caída de los márgenes que no podría generar suficientes beneficios para cubrir las fuertes provisiones de morosidad y puedo seguir pero no les voy a aburrir estas afirmaciones como estas a favor total y absolutamente de las cláusulas suelo eran realizadas

del banco de españa y aquí se ha dicho yo no lo pensaba decir porque dado el tono de las intervenciones sobre las posibles actuaciones de los gobiernos pero como el señor maneiro

en primer lugar el banco de españa a instancias del ministerio de economía emitió una circular

y que evaluaran si se hacían con criterios de legalidad y además ha fijado una serie de criterios

reclamaciones que durante el año dos mil doce fueron el doble que las del ejercicio del año anterior

pues como he expresado antes también teníamos responsabilidades aunque aquí

distintos partidos esta mañana hemos hablado de autogobierno yo misma he hablado de autogobierno

del mismo hay que es bueno defender las competencias pero es bueno también hacer un buen ejercicio de esas competencias y yo creo

de las funciones que tenía kontsumobide luego lo que a partir de ahora le estamos pidiendo a kontsumobide que haga lo podía haber hecho perfectamente antes nosotros estamos a favor de esta iniciativa y estábamos a favor de la iniciativa original y vamos a votar también a favor

enmienda transaccional no la voy a desmenuzar porque ya se ha hecho aquí y porque estamos de acuerdo con lo que se dice pero únicamente poner de manifiesto una cuestión que a veces es una pena una lástima que nos ocurran determinadas soluciones

poner en marcha una serie de soluciones que si se hubieran puesto en marcha cuando uno estaba en el gobierno podría haber producido unas consecuencias muy diferentes porque como decía kontsumobide no tiene

y si esta iniciativa es útil y va a ser útil y por eso la vamos a votar por qué no se puso en marcha antes porque nada ha cambiado se podía haber puesto en marcha perfectamente las fórmulas legislativas las herramientas legislativas eran

evitado al conjunto de la ciudadanía un sin fin de problemas que se han originado por acción o por omisión ojalá ojalá que iniciativas como estas se hubieran puesto en marcha antes porque el conjunto de los ciudadanos
lo hubieran agradecido enormemente nada más y muchas gracias eskerrik asko llanos

no creo que las cláusulas suelo sean objeto de poesía pero sí voy a utilizar el refranero cuando vea las barbas de su vecino pasar ponga las suyas a remojar y sabe por qué le digo esto porque ibarretxe también negó la crisis

el que tuvo que rehacer un presupuesto en el año dos mil nueve porque la crisis ya estaba

cada uno nos toca lo nuestro pero señor tellería le voy a decir una cosa estoy contenta estoy contenta porque el acuerdo es bueno y sabe lo que le digo que ojalá tenga efectos pronto

dejemos de hablar de cláusulas suelo porque la renuncia de derechos no es posible porque constitucionalmente los derechos quedan garantizados y son indisponibles e inalienables lo he dicho bien

con mi sentencia de muerte porque yo tengo derecho a la vida y entonces con eso ya le he dicho todo

nació de una proposición de ley socialista y lo puso en funcionamiento un gobierno socialista y fue la directora de kontsumobide de un gobierno socialista quien tuvo a bien sancionar una caja en el año dos mil doce y su sanción fue avalada por como he dicho el juzgado de contencioso administrativo

por lo tanto qué se nos puede reclamar a los socialistas nada señor maneiro de verdad podemos meter a los notarios a los abogados

la clave está en eliminar las cláusulas suelo señor maneiro si lo que queremos es eliminar las cláusulas suelo no queremos que haya cláusulas abusivas usted tampoco no queremos que haya cláusulas suelo y por eso desde las instituciones lo que tenemos que hacer

de control legales y administrativos para contribuir a ello dentro siempre de nuestro marco competencial y le voy a decir una cosa que seguro que usted estará de acuerdo conmigo porque alguna que otra vez se le he oído decir tenemos siempre que tener presente que los bancos han sido rescatados por las instituciones públicas con dinero de los ciudadanos cuarenta mil millónes de euros

y por eso entiendo que los ciudadanos también entienden que las instituciones deben ser exigentes con las entidades financieras y deben

que eliminar las cláusulas abusivas de sus contratos y eso no lo décimos solo los socialistas lo dice también la jurisprudencia que está siendo ejemplar en esta cuestión

es un buen instituto que nació con un gobierno socialista y claro que sí el gobierno nacionalista lo tiene que seguir utilizando

porque las personas son las que están sufriendo estas consecuencias yo les quiero decir una cosa creo que es un buen acuerdo creo que si el gobierno nacionalista lo lleva pronto a cabo tendrá pronto sus efectos y eso es lo que nos interesa y lo más importante es que las personas reciban

agradezco la sensibilidad de todos los grupos en esta cuestión y el apoyo alcanzado en el acuerdo y bueno voy a terminar diciendo que aquí todo el mundo hace alusión al psoe a zapatero y al grupo socialista para cosas malas bueno pues yo voy a contar una cosa buena el partido socialista obrero español

de los diputados una proposición de ley reguladora de las cláusulas suelo en los contratos del prestamo hipotecario y esto está
vigente por lo tanto veremos a ver cuál será la posición del resto de grupos por mi parte nada más y muchas gracias eskerrik asko sarasua andrea eh bilduk ez du hitz egin behar pinedo andreak

señora sarasua cuando nos iba a contar una cosa buena y ha empezado que el partido socialista creía que iba a decir que el partido socialista había vuelto

se me ha ido por un momento la cabeza en cualquier caso

ustedes montaron kontsumobide e hicieron la pnl de kontsumobide pero

entonces asfixiaban y no ahora que ya prácticamente no existen debido a las sentencias por qué ahora vamos a hacer un plan sobre unas cláusulas que prácticamente han quedado desaparecidas bien

en cualquier caso le quiero recordar que

alabando y mandaba el señor ordóñez entonces alabando las cláusulas suelo y defendiendo las cláusulas suelo

por otro lado no me voy a obsesionar con los notarios

no me hace falta pero sí le voy a recordar una cosa una orden ministerial

señaló en una orden ministerial de octubre del dos mil once señaló que los notarios deben informar entre otras cosas de si se hubieran establecido límites a la elaboración de tipo de interés como cláusulas suelo

en particular el notario consignará en la escritura esa circunstancia advirtiendo expresamente de ello al cliente y en una ley que están ustedes en trámite de aprobar el partido socialista en andalucía

dice me lo he traído porque me lo acaban de mandar a mí también me mandan cosicas

deberán dirigirse al sitio competente en consumo de la junta de andalucía ellos deberán ir directamente a la junta de andalucía a consumo se lo digo porque hay soporte jurídico suficiente

punto nada más en definitiva estamos satisfechos de haber firmado esta transacción no lo dude

porque hemos sabido aunar voluntades y ceder en nuestras proposiciones las cuales no pasan al olvido

no me preocupa al contrario me satisface haber llegado a este acuerdo porque como dijo hesse hermann solo se tiene miedo cuando no se está de acuerdo con uno mismo

no preguntemos si estamos plenamente de acuerdo si no tan solo si marchamos por el mismo camino yo creo que sí muchas gracias eskerrik asko tellería jauna

muy brevemente hombre yo aquí he de confesar que una se siente fuera de lugar por dos motivos una porque nunca cita a nadie

a ningún escritor y porque no me mandan cosas

de otros estamentos y una aquí tiene que salir con los papeles y con

lo que ha escrito y ha recogido mientras los demás

para no ser menos que el resto de los grupos isiltasuna mesedez bien y yo simplemente
pues por resumir lo que decía en la primera intervención

me parece perfecto iniciativas como esta de hecho ya he dicho

a votar a favor me parece perfecto la iniciativa no sé si que con ese espíritu renovado del que han salido los socialistas de la conferencia han presentado ahora en el congreso me alegro pero es que es cierto y yo eso lo decía en la primera intervención es que como bien ha dicho el señor tellería

que es que yo solo le he leído una pero es que había más y no me resisto a leérsela la banca busca recuperar con estas cláusulas se refería a las cláusulas suelo los costes mínimos generados por estos productos en momentos de caída muy pronunciado de los tipos de interés por lo que consideramos que se respetan los principios de prudencia y terminaba expresando en su informe que remitió al senado

porque son positivas desde el punto de vista del coste medio para los clientes bancarios

y esto que es difícil de creer lo decía

por como he dicho antes por primera vez y de forma unilateral por el partido

suelo si el propio gobernador del banco de españa reconocían que eran absolutamente estupendas y absolutamente indicadas para garantizar el acceso a la vivienda y por lo tanto en absoluto abusivas y señora sarasua yo pretendía repartir

y de la participación y de la actuación que kontsumobide podía haber tenido para evitar esta situación

pero como usted se la ha otorgado para el partido socialista en exclusiva

la crearon ustedes la dirigieron ustedes y todo lo hicieron ustedes y ha liberado de total y absoluta responsabilidad al grupo nacionalista cosa que le agradecerán enormemente pues yo solo reiterarle lo que le he dicho en la primera intervención es una lástima que las ideas brillantes y ese borbotón de iniciativas al partido socialista solo se le ocurren cuando están en la oposición isiltasuna ojalá

y que vamos a votar a favor lo hubiesen puesto en marcha en ese momento porque así muchos ciudadanos tendrían esas cláusulas ahora anuladas y su situación desde luego económica muy aliviada

aunque hasta ahora la de kontsumobide ha sido suya pero ahora es del partido nacionalista vasco la asuma con

y de verdad pongan en marcha lo que se pone en esta iniciativa porque por eso la vamos a apoyar consideramos que es buena para evitar
situaciones lamentables como las que hemos tenido hasta este momento nada más muchas gracias eskerrik asko llanos andrea eztabaida amaituta

buenas tardes gracias señora presidenta señorías señor lehendakari esta va a ser una proposición no de ley mucho menos animada

pero igualmente importante va a ser un poco más ladrillo pero esperemos que por el acuerdo alcanzado sea breve también porque hablamos de condiciones de trabajo de personal de osakidetza

proposición no de ley que presenta el grupo popular vasco con una finalidad eminentemente técnica para ayudar a los trabajadores y a sus representantes

y para hacer que la administración también reflexione sobre la necesidad de clarificar y redimensionar los conceptos que afectan a las condiciones de los trabajadores de la sanidad pública vasca condiciones que muchas veces se mueven en la dispersión y se mueven en el marasmo normativo y sobre todo en esta cuestión en la sanidad y en las condiciones de trabajo históricamente la regulación de las

se ha producido en algunas ocasiones pero en otras no mediante normativas convencionales pactadas en el seno de la mesa sectorial de sanidad a veces con unos sindicatos a veces con otros de hecho el acuerdo para el periodo dos mil siete dos mil nueve solo logró la adhesión de un sindicato el sindicato médico

doscientos treinta y cinco barra dos mil siete de dieciocho de diciembre por el que se aprueba el acuerdo regulador de las condiciones de trabajo del personal de osakidetza para los años dos mil siete dos mil ocho y dos mil nueve

al texto mencionado de un nuevo acuerdo alcanzado en la mesa sectorial esta vez el catorce de marzo del dos mil ocho mediante un mecanismo muy poco fino jurídicamente que consistió en adosar al texto inicial publicado el treinta y uno de doce del dos mil siete el

provocando errores porque ya existía en el documento inicial tres anexos rotulados con números romanos y un anexo adicional

modificaba varios aspectos del texto precedente así que ustedes se pueden dar cuenta de lo complejo de la situación desde el dieciséis de junio del dos mil ocho hasta el veintisiete de mayo del dos mil trece fecha de publicación en el boletín oficial del país vasco

el nuevo ejecutivo ha venido a modificar parcialmente una vez más el acuerdo de regulación de las condiciones de trabajo del personal de osakidetza

estamos viendo de modificaciones las numerosas modificaciones del acuerdo dos mil siete dos mil nueve han venido doblemente exigidas por un lado por la publicación de disposiciones legales de rango superior incompatibles con su texto como también por el hecho de que el propio acuerdo prevé en su artículo tres que si bien podrá tener una vigencia

y accidentalmente hasta la entrada en vigor de un nuevo acuerdo que en su caso pueda venir a suscribirse cuestión por cierto que hoy a la vista de las circunstancias y de la actitud sindical parece arto improbable a corto medio e incluso largo plazo entre las modificaciones de la

leyes autonómicas decretos instrucciones circulares acuerdos del consejo de administración de osakidetza de larga y prolija e innecesaria numeración

en el seudo texto oficial que se puede obtener de repetido acuerdo regulador de las condiciones dos mil siete dos mil ocho dos mil nueve en la página web oficial

bien los empleados públicos como en general todos los trabajadores por cuenta ajena tienen derecho a que los aspectos centrales de la regulación de sus condiciones de trabajo sean claros sean diáfanos sin incertidumbres sin márgenes o riesgos de interpretación

el estatuto de los trabajadores sino en la globalidad de sus condiciones de trabajo hoy en día esta imprescindible claridad no existe en las condiciones de trabajo de los trabajadores de osakidetza para la gran mayoría de los empleados públicos del sector sanitario resulta prácticamente imposible conocer

por lo que se hace absolutamente imprescindible resolver esa carencia del sistema

único de toda la regulación de las condiciones de trabajo en el que

que se han producido en el contenido material del acuerdo inicial publicado en el boletín oficial del país vasco en dos mil siete

entendemos que tiene que ser una manera integrada de una manera concordada este documento

en la que determinados contenidos han sido desplazados variando de ubicación provocando errores que se aprecian a simple vista desde la perspectiva de la evolución

en todos estos años etcétera por otra parte bien pudieran estar previstos nuevos cambios inmediatos en la materia en la línea de la oferta de veintinueve de abril de dos mil trece de la dirección de recursos humanos del ente público a los sindicatos en el ámbito de la mesa

asimismo sería menester valorar cuál puede ser la más adecuada denominación del texto resultante visto que el

tiene ya muy poco de acuerdo es más si en su momento el acuerdo se limitó a sindicato médico

desacuerdo general y una confrontación sindical intensa y extensa contra los recientes cambios por lo que el nuevo texto resultante

no acuerdo bien podría denominarse regulación marco condiciones o denominaciones similares hemos llegado a un acuerdo con el grupo nacionalista con el grupo que apoya el gobierno agradezco al señor orbegozo sus gestiones y en ese sentido pues lo que hacemos es profundizar en la línea de la claridad de un texto

que diga las cosas claras que unifique y que integre desde luego toda esa normativa a la que nos hemos hecho referencia

pero que incide en las condiciones efectivas de trabajo y que se debe dar claridad sobre ella el texto de la enmienda de transacción dice los siguiente que el parlamento vasco inste al departamento de salud del gobierno vasco a presentar en el plazo de cuatro meses un documento ahí está la clave en el que se refunda las condiciones laborales

encontramos que ese trabajo lo debe hacer el gobierno lo debe hacer

efectivamente esa labor de clarificación está en su mano y desde luego eso afectará beneficiosamente a los trabajadores a sus representantes a quienes tengan que interpretar

también hemos recogido alguna sensibilidad de la que venía reflejada en

insuficiente pero yo creo que lo importante es la primera parte

en el segundo párrafo décimos que el parlamento vasco insta al gobierno vasco a convocar a la mayor brevedad la mesa sectorial de sanidad para continuar con la negociación de las condiciones laborales del personal de osakidetza

siempre tendrá que reclamar o deberá reclamar y sobre todo a la administración y los sindicatos también deberán de coger

he dicho que se han manifestado en las enmiendas y si bien será necesario ser más ambicioso en lo que es el trabajo de hecho en esta cuestión

que efectivamente la clave de nuestra iniciativa está

refundido tan necesario y que es tan exigible y desde luego con los que trabajan con las piezas y los elementos jurídicos a la hora de interpretar las condiciones de trabajo del personal de osakidetza pues lo necesitan

muchos textos aparte de lo que hemos indicado antes del decreto

está el decreto ciento seis barra dos mil ocho que aprueba un acuerdo de la mesa sectorial que

acuerdo regulador el decreto nueve barra dos mil doce sobre aplicación de medidas de reducción de gasto público en desarrollo de la ley seis barra dos mil once de veintitrés de diciembre por el que se aprueban los presupuestos generales

el decreto ciento setenta y tres barra dos mil trece en definitiva una serie de normas una serie de decretos decreto trescientos quince barra dos mil trece de modificación del decreto por el que se aprueba el acuerdo regulador de las condiciones de trabajo

circulares un montón de circulares que se suman a todo este marasmo normativo

circulares más que aparte de los real decreto el real decreto ocho barra dos mil diez el real decreto ley

en definitiva una serie de cuestiones que algún día habrá que clarificar pues bueno pues hoy le vamos a dar cuatro meses

para que refunda en un texto todo este marasmo normativo muchas gracias eskerrik asko barrio jauna zuzenketak aurkeztu dituzten taldeetara pasatuz eh bilduko

bi mila bederatzikoa dugu zehatzagoak izateko acuerdo regulador de las condiciones de trabajo del personal de

servicio vasco de salud para los años dos mil siete dos mil ocho y dos mil

erdibidekoan aipatzen duzue continuar con la negociación de las condiciones laborales del personal de osakidetza continuar

eta lan baldintzen negoziaketetan por lo tanto entendemos que es necesario un texto actualizado de las condiciones de trabajo

ya se está elaborando ese texto tendrá que recoger el conjunto de condiciones

cuáles son de la mejor manera posible o de la manera más accesible eta

es un plazo prudente eta konfidantza osoa daukagu ba jaurlaritzak

señora presidenta si me lo permite desde el escaño para decir que el grupo parlamentario socialista coincide con lo

efectivamente todo aquello que esta es una iniciativa de carácter eminentemente práctico dirigido

las condiciones de trabajo dirigidas la información dirigida a los trabajadores porque es verdad que tal como ha manifestado el proponente en la actualidad es una maraña

a favor de esta transacción y la segunda parte también nos parece interesante puesto que las condiciones laborales acordadas constituyen una condición mucho más favorable para el desarrollo de los objetivos

que una condición impuesta como puede ser un decreto por tanto instar al gobierno a flexibilizar

al objeto como décimos de alcanzar ese necesario

barrio jauna zurea da hitza gracias presidenta con su permiso desde el escaño

la sensibilidad de los grupos en relación con esta cuestión efectivamente una cuestión técnica una cuestión práctica una cuestión

clarificación necesaria sin duda alguna y bueno

tiene trabajo si lo está haciendo mejor pero bueno en cuatro meses tendrá que realizar un trabajo que es importante porque la necesidad es imperiosa y a la señora ubera decirle que efectivamente se podía haber sido un poco más

a convocar a la mayor brevedad la mesa sectorial de sanidad para continuar con la negociación de las condiciones laborales de trabajo del personal

está ahí y desde luego siempre se puede hablar de continuar en el ejercicio de la labor política de un gobierno porque efectivamente es continuar históricamente hay que continuar

de preocupar hay que denunciarlo pero en cualquier caso yo creo que lo importante es que el parlamento vasco hoy le dice

brevedad convoque esa mesa sectorial y ahí se van a hablar de los temas

a usted le preocupan que a nosotros también y que sobre todo preocupan al personal de osakidetza yo creo que

de que la redacción pueda ser un poco más exigente pero el fondo es absolutamente claro